que en los centros de salud en las consultas de endocrinología de los hospitales de osakidetza se proporciona a los diabéticos

que necesitan para el control de su enfermedad estoy absolutamente seguro desde el departamento de salud ni ahora

se ha dado ninguna instrucción que vaya en la línea de reutilización

nuestros profesionales son los que mejor conocen a sus pacientes y con los que con mayor celo velan por su seguridad y su salud además los profesionales sanitarios que entregan este tipo de material conocen

se indica que son se un solo uso el departamento de salud

ezagutzen dut se da la circunstancia también de que en ocasiones se les proporciona a los pacientes

en definitiva estamos ante una práctica que presenta una gran variabilidad probablemente ni siquiera en todos los sitios estandarizado el número de material que se da a cada paciente y depende de la relación

del paciente con la enfermera de su equipo de atención primaria del paciente con su endocrino o médico de familia respondiendo directamente a la pregunta que me hace le diré que sí

siempre lo hemos hecho no nos consta que ni en esta ni en anteriores legislaturas

nos ha llamado poderosamente la atención que no sea una queja

pero bueno por otro lado transmitirle que yo no me he negado a recibirles me he negado a compartir una rueda de prensa en la que no tenía claro qué era lo que se iba a decir nada extraño por otra parte

no escatiman recursos para los pacientes cuando los consideran necesarios si se ha tomado usted el trabajo con los pacientes que estoy seguro que sí

que los profesionales están cualificados y comprometidos con los pacientes y por terminar le diré que una nota que remitió el ministerio de sanidad y políticas sociales al respecto de la reutilización

a los profesionales al conjunto la pasada legislatura en mayo del dos mil once eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian maneiro jaunak dauka hitza sí muchas gracias señor consejero

señor darpón ya es la última y además es que

podía haber no existido o haber sido retirada pero no es para fastidiar

que cuando algo el gobierno no hace bien pues también una pregunta parlamentaria sirve para que lo corrija o sea que en ese sentido yo creo que es más la pregunta y la respuesta del consejero que seguramente

no irregularidad disfunción y lo que pasa es que a veces las actitudes también

el departamento de sanidad más concretamente la dirección de salud pública

el próximo día veintisiete la primera reunión del consejo asesor de drogodependencias la primera de esta legislatura a tratar temas que incompeten al parlamento como la nueva ley de adicciones etcétera el día veintisiete es jueves por la mañana jueves por la mañana

estaba convocada la reunión claro cinco miembros del consejo

de esta cámara y además es que se nos pidió a la cámara la designación de los miembros porque iba a haber el consejo asesor de drogodependencias esta cámara con celeridad nombró a sus cinco miembros

y efectivamente curiosamente nombra la cámara a los cinco miembros y se convoca el día veintisiete a la mañana el consejo asesor de drogodependencias bueno eso puede ser un error que se pone de manifiesto

desde esta cámara se pone de manifiesto que mire les dice

es jueves y hay pleno del parlamento vasco y bueno no parece una buena idea sobre todo por los temas que se van a tratar que

el consejo asesor de drogodependencias se mantiene y se dice que ya les mandaremos la documentación

ya veremos lo que hay porque la agenda de la señora directora está muy cargada y no se puede cambiar

y efectivamente eso lo identificamos no nos gustó yo lo he comentado con otros portavoces parlamentarios efectivamente esa actitud por eso mismo fue la pregunta

ayer mismo el departamento la dirección

desconvocó la reunión del día veintisiete y la convocó para el día doce de julio bien eso está ahí no sé cómo ha controlado usted este es que el asunto ya que me interesa un poco es cómo ha controlado usted esta situación

qué ha pasado en el departamento para que esto fuese así es decir para que una vez puesto de manifiesto el problema sin embargo se persistiese en no hacer caso
al parlamento muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

presidente jauna legebiltzarkideok la verdad es que es de agradecer casi terminar la semana con este

yo no fui consciente hasta ayer a la mañana de la fecha en la que estaba convocado el consejo asesor de drogodependencias

es un consejo asesor numeroso y efectivamente la dirección de salud pública no demasiado acostumbrada a las lides parlamentarias

simplemente cuando me enteré que había ocurrido que lo convocaban

pues mandé cambiar la convocatoria bien es cierto que tuve que enterarme porque tenía esta pregunta hoy

ahora a continuación lo hubiera hecho con igual gusto y desde luego

de que nos parece muy importante la participación parlamentaria

dado que además como saben en esta legislatura pensamos abordar la ley de adicciones

al señor consejero las explicaciones y bueno el hecho de ver que fue consciente ayer y ayer efectivamente desconvocó el consejo asesor y lo convocó para el próximo día doce de julio efectivamente yo quiero llamar la atención es un consejo importante y de que según el departamento ha anunciado va a haber iniciativas importantes en materia de adicciones y de drogodependencia y algunas de ellas se llevan o sea que en ese sentido la sensibilidad hay que tenerla desde el principio y algunas actitudes pues esperemos que se corrijan y le agradecemos